señora consejera hablamos de movilidad sostenible y hablando de movilidad sostenible tengo que decir

original y novedosa del gobierno el plan renove para

lo copian pero lo hacen tarde y mal cuatro meses de retraso en actuar ante una situación crítica para el sector de la automoción y en vitoria al menos

casi a la par la ministra del ramo también ha reculado de aquello que decía del diesel tiene los días contados ha pasado a dar marcha atrás en todas las medidas que

pedíamos en nuestra moción y que también votaron en contra

estas medidas en octubre hubieran evitado muchas de los parados que se han generado en este tiempo y también un alto porcentaje de las pérdidas del sector de la automoción en aquella moción que presentamos en octubre en el punto cuatro también instábamos al gobierno vasco a que

tanto desde el punto de vista medioambiental como social y económico usted el veinticuatro de septiembre

nos comunicaba en esta cámara la declaración de compromiso del gobierno vasco con la movilidad sostenible que efectivamente

que requiere de la coordinación de numerosos instrumentos y herramientas en los planos

hacía referencia a las distintas medidas impulsadas por el gobierno y hacía referencia al plan director del transporte sostenible a la estrategia energética dos mil treinta a la estrategia de cambio climático dos mil cincuenta y que decía

que de manera más efectiva contribuya a desarrollar el modelo de movilidad del futuro más eficiente y actual hacía referencia a la ley de movilidad sostenible de euskadi y que efectivamente figura en el calendario legislativo aprobado por el gobierno vasco y que según figura en el acuerdo de gobierno tenía prevista su entrada en esta cámara en el cuarto trimestre de dos mil dieciocho la realidad es que el proyecto de ley de movilidad sostenible no ha llegado a esta cámara ni al consejo de gobierno

del proyecto de ley de movilidad sostenible y usted contestaba el veintisiete de noviembre que esa orden tenía fecha de veinte de noviembre qué casualidad señora consejera esta circunstancia seguramente tiene su justificación en que dado el celo profesional del señor arbulo se ha adelantado con la pregunta y de ahí esta coincidencia

nos dé otra justificación está claro que no han cumplido ni de lejos el compromiso adquirido señora consejera y el procedimiento de inicio de este proyecto coincide justo con las fechas que expira el plazo que se había comprometido el gobierno entregar este proyecto en esta cámara

que se exige nos decía la señora consejera aquel veinticuatro de septiembre que la nueva ley de movilidad sostenible se tramitará

qué entiende la señora consejera por tramitar porque igual tenemos conceptos distintos

prevé una inversión en torno a los ochocientos cuarenta millónes de euros hasta dos mil veinte

que es uno de los pilares o así lo anunció de este proyecto de ley

cinco mil coches ecológicos entiendo que son eléctricos circularán por las carreteras vascas

o es otro concepto puede ser que sean de poco recorrido y por lo tanto solo

con la inversión prevista para el tren de alta velocidad pues trescientos cuarenta millónes sumaban esos ochocientos cuarenta que usted nos decía que era el sustento de la ley de movilidad sostenible

otro reto de esta ley también nos decía que era la apuesta por la intermodalidad en las estaciones la conexión entre tren

y la mejora de las mercancías las nuevas plataformas multimodales pero señora consejera estas inversiones del tren de alta velocidad las inversiones previstas paras las estaciones para los soterramientos

los pilares de la ley que usted hacía referencia

insistía usted en que trabajan por un modelo de movilidad sostenible pero que

política de estado no traiga consigo retrasos en la y vasca y señora consejera los

no son de ahora los retrasos están desde el mes de junio y usted así lo reconoció ya lo aclaramos en su día y la inestabilidad política la eligieron ustedes además quiero recordar que con alevosía y premeditación

estrategia por la que se nos han esfumado quinientos millónes de euros de inversión para el país vasco y una parte muy importante son para la y vasca y para

se lo he dicho en otra ocasión y se lo digo ahora y es que lo tenemos que decir son corresponsables de esta situación ustedes eligieron

la incertidumbre ustedes tenían un presupuesto con una estabilidad

y esta es la consecuencia eso que dicen ahora que se genera un retraso

y todo eso por qué ha sido sencillamente ha sido por su mala cabeza desorientada ambición y ha provocado que estos quinientos millónes de euros que son imprescindibles para continuar con esa infraestructura que nosotros la consideramos prioritaria

de tal manera que la movilidad sostenible entendemos si estos eran los pilares de la ley pues se está

decía señora tapia hace pocos días que la falta de rigor en la comunicación genera inestabilidad lo decía usted dirigiéndose

usted vive de anuncios porque

hacemos poco de cuatro leyes que se comprometió a traer a esta cámara esta legislatura dos ya estaban hechas anteriormente han venido tal cual el trabajo que les ha aportado esta legislatura ha sido cero luego la modificación de la ley de desarrollo que

todavía dos meses para entrar en esta cámara ya lo veremos y esta la ley de movilidad sostenible todo el año dos mil dieciocho anunciando esta ley y no hay nada

y señora consejera este proyecto de ley va a requerir de un trabajo

con los planes de movilidad de ayuntamientos y diputaciones tendrán algo que decir y estamos en un momento

porque las corporaciones de los ayuntamientos y las diputaciones van a cambiar en junio entonces qué plan tiene usted programado para acordar un texto de ley un anteproyecto que pueda venir a esta cámara en tiempo para que pueda ser aprobado esta legislatura

entonces señora consejera yo le pregunto cuál es el propósito del gobierno para planificar los tiempos y trabajos para elaborar el proyecto de ley de movilidad sostenible

señora lópez de ocariz lo decía usted vivimos en una sociedad con cambios constantes que se desarrollan a gran velocidad y también en el sector de la movilidad por supuesto

y estamos afrontando una transición hacia un modelo de movilidad que quizá hoy pueda ser desconocido y que tenemos que analizar también dentro de esta ley

de las administraciones del gobierno por supuesto pero también diputaciones forales y ayuntamientos facilitar esa transición hacía una movilidad sostenible que ponga en marcha acciones que logren vencer la situación actual

en muchos comportamientos privados también y para ello la sociedad privada sí pero también la administración pública tiene que realizar sus tareas

de tener un modelo de movilidad sostenible para el conjunto de euskadi teniendo en cuenta principios como siempre medioambientales sociales y económicos porque existen elementos transversales dentro de lo que es el ámbito de la movilidad herramientas dentro del ejecutivo vasco que permiten que se desarrolle de una forma adecuada euskadi además ha asumido el objetivo ha asumido la agenda

sin duda ustedes saben y alineamos políticas públicas para desarrollar una sociedad humanamente sostenible y económicamente sostenible necesitamos servicios esenciales bien planificados bien ejecutados un crecimiento sostenible y desde luego analizar todos y cada uno de los objetivos que se plantean en esa agenda y uno de los elementos principales es la lucha contra el cambio climático y no nos olvidamos y lo tenemos que ir introduciendo en todas y cada una actuaciones en todas y cada una de nuestras leyes planes programas y demás queremos desde luego establecer políticas que sean inclusivas seguras sostenibles

y que avancemos progresemos eliminando el gasóleo del transporte descarbonizando lo que es nuestra economía y descarbonizando todo lo que es nuestra actividad por ello usted ha hecho referencia a una serie de planes y programas que existen y no me quiero olvidar de ellos

director de transporte sostenible ya aprobado el plan estratégico de seguridad vial movilidad

la estrategia energética de euskadi también el plan integral de movilidad eléctrica y la estrategia vasca contra el cambio climático todos ellos tienen que

sus actuaciones con esta ley o esta ley con todas esas actuaciones estamos pendientes de poner en marcha la ley es cierto llevamos retraso sí

en marcha de esta ley de movilidad sostenible de euskadi que está en nuestro calendario de leyes que está en el acuerdo de gobierno tenemos que ser conscientes de que efectivamente tenemos una tarea pendiente euskadi no parte de cero tenemos muchas actuaciones en marcha pero tenemos que encontrar actuaciones alternativas acciones que nos permitan paliar esos elementos

socialmente ambientalmente económicamente hagan que el modelo se defina de una forma diferente y que nos haga transitar a un modelo diferente cada día en europa estamos observando

que van a modificar nuestras actuaciones y todas ellas las tenemos que considerar pero además requiere algo no poco importante que es la articulación de plazos y acciones que nos permitan entre todos poner en marcha una ley adecuada con la que todos nos sentimos suficientemente cómodos administración personas usuarias

de todos los niveles decía que la ley de movilidad sí estaba prevista para llegar a esta cámara en diciembre de dos mil dieciocho y que se nos ha retrasado es cierto

sin embargo no es porque tengamos un menor compromiso con nuestras actuaciones con la puesta en marcha de la ley sino que precisamente

analizando que también desde eudel desde los municipios se están introduciendo nuevas competencias y que hay más administraciones afectadas tenemos que ser capaces de

desde el punto de vista del transporte que garantice la movilidad económica y sostenible pero sobre todo eficiente y respondiendo a todas las necesidades sobre todo en personas pero también de mercancías tenemos que ordenar instrumentos procedimientos y demás y sobre todo evitar

esta ley en dos mil doce que planeó de alguna forma sobre las competencias forales y que generó muchos problemas

que estaban de alguna forma que eran incumbentes en este caso y es un escenario que queríamos evitar por tanto hemos tardado más porque hemos tratado precisamente de analizar todos esos informes y en consecuencia tratar de establecer una ley que tenga de inicio al menos el máximo consenso y que nos permita

reconocer el papel de las autoridades territoriales del transporte y de la autoridad del transporte de euskadi y tratar de compaginar esas competencias de la forma más adecuada posible

tiene los siguientes objetivos configurar un sistema de transporte integrado

esa diversidad de administraciones lo cual no es sencillo de implementar pero al menos nos ponemos de acuerdo en que así lo tenemos que hacer articular un sistema de relación

conocer cuál va a ser la relación entre todas esas administraciones que en cada momento se sientan incumbidas por esta ley priorizar el transporte público y colectivo sobre el transporte privado

contaminantes y menos emisiones de gases de efecto invernadero que tenga menos coste social promover un sistema público además cercano y óptimo desde el punto de vista de las personas usuarias que económicamente lo podamos sostener en el tiempo que no es baladí

fomentar métodos de transporte modelos de transporte que tengan en cuenta todos los efectos innovadores todos los efectos de la innovación sobre ellos mismos

impulsar un equilibrio territorial que nos permita garantizar las mismas condiciones a aquellas personas que viven en las grandes urbes o aquellas que viven

y que garantice esas condiciones de modernidad en qué situación de tramitación nos encontramos en este momento usted lo decía

un mes de una consulta previa que se ha realizado entre el veinte de noviembre y veinte de diciembre de dos mil dieciocho el día veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho firmé la

iniciada por tanto trámites hay muchos pero está iniciada y a partir de ahí

desde ese veintiuno de diciembre que firmé la orden de inicio automáticamente se envió a todos los miembros de la autoridad del transporte de euskadi que además tienen que validar esa ley tienen que analizarla la documentación de tal manera que en la reunión que tuvimos en enero ya como

explícita de forma amplia y se ha establecido una mesa de trabajo para analizar la propia ley dentro de la autoridad del transporte pero además

informe jurídico que nos ha permitido precisamente que este miércoles se haya firmado la orden de aprobación y que

traducida toda la documentación a euskera porque se había realizado en castellano lo tengo que también recordar en este momento se haya enviado a lo largo del día de hoy a esta cámara tras esa firma de orden de aprobación y ahora nos toca toda la tramitación administrativa que faltaba muchísimos informes todavía

del ministerio de fomento porque también está afectado en cuanto a transporte ferroviario de cercanías diputaciones y demás instituciones que nos permitan completar todos los trámites

de tiempo que tienen todas estas administraciones y todos los trámites hacia noviembre de este año dos mil diecinueve estará todo finalizado si somos suficientemente

por ese plan de financiación que tenían para la movilidad sostenible dos mil dieciocho dos mil veinte porque eso usted aquí lo anunciaba como una pata importante

esta ley por lo tanto me gustaría saber en esta situación eso que decían ustedes el otro día que ustedes ahora están en el objetivo de que la inestabilidad política del estado no nos traiga retrasos en la y vasca y es que parte de esta ley usted la soportaba sobre el desarrollo de toda la infraestructura en torno al tren de alta velocidad a las estaciones intermodales

nosotros entendemos que para esa movilidad de las personas y de las mercancías se requiere de unas inversiones muy importantes por lo tanto una cosa es el texto y otra cosa es qué financiación vamos a tener para que esa ley sea realmente bueno

eficaz porque usted me hace mucha gracia cuando hablan a la inestabilidad como si la inestabilidad hubiera caído del cielo la inestabilidad como le he dicho antes la eligieron ustedes

de nueve meses se dan ahora cuenta de lo retrasos retrasos que hay desde el mes de junio que usted ya lo reconoció aquí yo creo que han sido

han sido torpes a la hora de reaccionar y han sido torpes a la hora de reconocer que esta mala decisión

con quinientos millónes de euros que teníamos en la mano y que ahora se han ido a la papelera porque ustedes dejaron o separaron tiraron al gobierno de rajoy y se alinearon con un gobierno

y de ahí pues estamos en esa situación claro usted decía el siete de febrero decía

y reconoció la incertidumbre del sector del automóvil que es parte de la movilidad

se está paralizando reducir como objetivo las emisiones desde la neutralidad tecnológica que ya me gustaría que me explique

tecnológica estas incertidumbres nos obligan a estar vigilantes los próximos diez años y a hacer una planificación flexible ayer se aprobó en esta cámara una ley de sostenibilidad energética y desde luego

es muy exigente y el que no cumple es sancionado entonces señora consejera yo veo que usted hace muchos titulares de prensa muchísimos telediarios

pero no pasa del compromiso que anuncia al hecho y no se ve usted nos anuncia ahora un escenario de incertidumbre que puede ser que todo esto no sea como yo estoy anunciando que probablemente no va a ser porque si no tenemos la financiación difícilmente una ley que se sustenta en una financiación que acabamos

aparte de anunciar es ejecutar y es ser responsable y que usted

anuncia compromisos nos habla de millónes coge los millónes de aquí y los pone allí ahora sumo lo que me va a dar el gobierno de españa más lo que yo digo que voy a gastarme aquí

y va con los millónes como si fuesen manzanas de cesto en cesto y ahí estamos

estamos hablando de esto dos años y aquí estamos parados dos años

por lo tanto señora consejera paralelo al texto tiene que haber una programación económica

habla de financiación pero la financiación es imprescindible y por lo tanto los informes económicos tendrán que ser ajustados a la realidad

y señora consejera además de anuncios de telediarios

pues hay que ponerse a trabajar y a ejecutar y de verdad hasta hoy después de dos años su resultado es bastante flojo por no decir casi nulo

pero hasta hoy casi nulo eskerrik asko

millónes como manzanas decía usted ya me gustaría pero usted lo que hace es mezclar peras y manzanas

no descubre usted el mundo creo que a nadie de esta cámara cuando dice que

ya lo sabemos y precisamente la orden de aprobación se firma cuando existe la memoria económica no vamos a descubrir nada me mezcla usted el plan de movilidad eléctrica que llevaba un presupuesto

no esta ley es una ley cuya orden de aprobación se ha firmado que lleva los objetivos que tiene que lleva una memoria económica y me mezcla usted

establecer determinados elementos en cuanto a cumplimiento de emisiones de ce o dos

contaminantes y no favorecer a ninguno de ellos sino establecer una neutralidad pero bueno se lo puedo explicar más despacio pero perdóneme que le diga mire

mis hijas que no les gustara que las cite hoy pero suelen decir a veces cuando alguien no sabe qué hacer dicen estos se han reunido por la mañana y yo creo que el grupo del partido popular se ha reunido esta mañana para tomarse un café antes de venir a esta cámara

y el mensaje que tocaba hoy uno detrás de otro y me toca el señor sémper bueno estoy deseando escuchárselo a él también porque seguro que lo dirá el mensaje de hoy es ustedes se equivocaron o sea bueno ya de verdad que son ustedes un poco cansos pero

lo que hay que hacer es seguir trabajando y si quieren trabajar por este país además de mirar

hagan propuestas concretas y trabajemos todos en esta cámara

de los presupuestos de los que hablamos y de la ley que se tiene que aprobar en esta cámara

vamos a una vez que llegue la ley trabajarla desde aquí les recomiendo que de verdad nos centremos en esta cámara y no en otra eskerrik asko eskerrik asko tapia

entre ellas planes de renovación y otras medidas para acelerar la introducción de vehículos con combustibles alternativos vehículos con combustibles alternativos

dejo de lado la parte del debate medioambiental creo que no resiste ni el más mínimo análisis

y yo le digo su plan es testimonial el año pasado

usted pone cinco millónes de euros o manzanas lo que sea como mucho

ayudar durante un año supondría cien millónes de euros y eso no va a pasar porque se les descalabra el presupuesto el suyo y el del eve le añado su plan es fugaz el año pasado se vendieron de media ciento dieciséis vehículos al día y esto da para dos mil quinientos vehículos así que a ese ritmo el plan puede durar unos veinte días que van a ser menor porque la gente se va

además su plan es regresivo a usted le parece normal lanzar un plan de ayuda

si esto fuera poco su plan es descoordinado ustedes dijeron que las ayudas iban a ser compatibles con otras y dos días después el psoe en madrid saca el plan moves de vehículos alternativos

las subvenciones reguladas en este real decreto no serán compatibles con otras subvenciones o ayudas

que iba a ser acumulable sin saber lo que iba a sacar el gobierno del estado

para hacérselo mirar estando los socialistas en ambos gobiernos o bien

y si lo sabían simplemente nos han mentido lo cual es aún peor por este motivo su plan no fomenta la movilidad alternativa como ha aprobado este parlamento ustedes dan hasta tres mil euros por la compra de vehículo eléctrico

y no son acumulables el que quiera coche eléctrico se va acoger al plan de madrid así que con su plan todas o casi todas las subvenciones

y para rematar todo está siendo caótico ustedes anunciaron que el plan se pondría en marcha en abril a finales de marzo

y lo han adelantado un mes pero seguimos sin tener el plan se han notado un montón las prisas porque el objetivo

el objetivo es otro y tal vez lo consigan porque habrá

un repunte de ventas en la estadística hinchada fugazmente con el dinero de todos

es jugar a corto en lugar de buscar soluciones que realmente impulsen la evolución del sector

en otras palabras señora tapia usted está haciendo algo muy feo está lanzando una precampaña electoral con dinero público

a la que mayoritariamente no le va a llegar el plan en mi pueblo se llama demagogia así que para conseguir lo que quiere le sugiero que vaya bajo palio con esas manzanas millónes y vaya repartiendo monedas
porque le sirve para lo mismo nos cuesta menos y es más ecológico eskerrik asko otero jauna

josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

erabiltzen duten ibilgailuak erosteko besterik ez tenemos un plan integral de movilidad eléctrica lo ha aprobado su gobierno no lo ha aprobado la oposición no lo ha aprobado este grupo pero es un plan

en ese plan aparece en el plan de acción la primera medida incentivar la adquisición y uso de vehículos eléctricos en el país vasco y este plan renove no va a incentivar la adquisición de ni un solo vehículo eléctrico lo ha dicho el señor otero

en ese plan aparece como objetivo que tengamos en dos mil veinte es decir el año que viene cuatro mil ochocientos vehículos eléctricos ahora mismo tenemos mil cien en las calles

se podría llegar a ese objetivo pero no se va a vender ni uno solo otro de los objetivos de este plan integral era que las administraciones públicas vascas realicen acciones ejemplarizantes de uso del vehículo eléctrico

a gas no eléctricos a gas a qué están jugando a no cumplir su propio plan

su plan es descoordinado yo creo que no tiene nada de descoordinado está perfectamente coordinado

cual la transición energética es una amenaza y no una oportunidad y esa parte de la industria del automóvil tiene dos opciones ante los cambios que se avecinan o sufrir esos cambios inevitables el abandono de las energías fósiles empieza a ser un hecho si ustedes quieren ayudar a mercedes ayúdenles a vender sus vehículos eléctricos no a aliviar el stock de vehículos de gasoil que no pueden vender ya en otros países

pero que los vehículos eléctricos se pueden utilizar aquí y con ese plan que ustedes acaban de presentar no se va a vender ni uno solo ha dicho el otro día el representante del clúster de la automoción

qué pasa que no tenemos dependencia del petróleo de oriente medio vamos a ser dependientes de una u otra manera el asunto es cómo hacemos esto cómo lo planificamos y no podemos

bien planificar los cambios eso es gobernar y lo que ustedes están haciendo con este plan renove es actuar

y a remolque de las circunstancias coyunturales de cada momento no podemos

con planes renove que ni sirven para la transición energética del país ni sirven para ayudar

muchos puntos muchos trabajos que realizar y entre ellos sí hay vehículos privados pero también hay la apuesta que se hace ayer en la ley por la adquisicion de vehículos eléctricos y no contaminantes también en el transporte público con la puesta en marcha de la línea

también trabajamos el tema de las baterías tanto desde el cic energigune como desde cidetec con el centro mubil en gipuzkoa luego estamos trabajando también en los elementos de baterías que van a ser imprescindibles para esa transición pero también trabajamos con el gas porque

utiliza o se ha prohibido ya la utilización de cualquier vehículo privado que no sea eléctrico

y que contamina cada uno de esos barcos muchísimo más que todos los vehículos que andan en cada una de las islas luego también tenemos que trabajar el transporte marítimo y el transporte a gas en el transporte marítimo y también ahí estamos trabajando pero es que

privado y ahí hay un plan perfectamente establecido con el sector de automoción estamos trabajando con todo el sector

insisto no solamente vehículo privado también vehículo de transporte público

ordenada y precisamente por eso además se ha firmado un convenio de colaboración por ejemplo con la empresa gestamp para qué

más i asociada a vehículos más ligeros y a electrificación de vehículos aquí en euskadi luego estamos trabajando en todos los ámbitos en todos y cada uno y esa transición se tiene que hacer de forma ordenada

ahora bien también tenemos que ser conscientes de cuando por ejemplo

y ha establecido una serie de limitaciones para que entren vehículos a madrid

sino que entren aquellos que tienen una calificación que determina cuántas emisiones gases de efecto invernadero es decir de ce o dos y cuántas emisiones de contaminantes tienen un vehículo a gasoil y un vehículo de gasolina con una etiqueta verde pueden entrar también en madrid luego esa transición la tenemos que hacer con cuidado

hacia una menos contaminante y menos carbonizada que es de lo que estamos hablando y eso se hace estableciendo diferentes tipos de actuaciones y no solamente una y de ahí vuelvo

tener un sistema en el que estemos trabajando de forma ordenada y que además sea con neutralidad tecnológica que cualquiera de las tecnologías que sean poco o nada contaminantes sean utilizadas para llegar
a ese escenario totalmente descarbonizado eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea

buenos días a todas y a todos señora consejera ya entiendo que es un poco latoso venir aquí los viernes a responder a la oposición que nos da por preguntar lo que queremos no lo que a usted le apetece esto es lo que tiene la oposición que

y controlar su gestión yo le quiero preguntar señora consejera por algo que entiendo que le molesta o que no le apetece hablar sobre lo que no le apetece hablar que es el aeropuerto de san sebastián

encargada cuyo objeto social es la promoción del aeropuerto de san sebastián habida cuenta de los resultados

y también en términos comparados pues no parece que ortzibia esté dando muy buenos resultados yo lo que quiero preguntarle señora consejera es que qué hacen en ortzibia

que ya que promocionando no consiguen ayudar al aeropuerto tampoco en relación con otros aeropuertos

eskerrik asko presidente andrea señor sémper no me preocupa lo más mínimo venir y responder a todo lo que ustedes estimen oportuno

algunas preguntas que serán más complicadas y otras más sencillas pero no tengo ningún inconveniente en responder a ninguna ahora me llama muchísimo la atención que

soy responsable de infraestructuras no en la legislatura anterior en esta el partido popular y usted en persona nunca se han preocupado ni en pleno ni en comisión

nunca nada por el aeropuerto de donostia san sebastián

ustedes como grupo nunca y usted en persona nunca ahora bien se le ocurrió y digo ocurrió la pasada sesión de control estaba haciendo una pregunta al señor lehendakari me miro y dijo mira voy a preguntar por el aeropuerto la próxima ahora que soy candidato voy a preguntar pues

hace algunas de las actuaciones que desde luego siendo

y se dedica a hacer crecer los pasajeros a solucionar algunos problemas que existen con la pista y desde luego está dando muy buenos resultados la colaboración institucional

ya entiendo señora consejera que a usted le gusta hablar de competencia pero permítame que yo le hable de incompetencias su gobierno su gobierno

como usted bien sabe su partido el partido que sustenta su gobierno el partido nacionalista vasco junto con el partido socialista están en contra de la ampliación de la pista del aeropuerto de san sebastián

continuamente se desvían vuelos a madrid fundamentalmente

se desvían a bilbao las frecuencias de vuelos a madrid descienden qué sucede qué hacen los de alrededor

qué frecuencias ha incorporado y que destinos ha incorporado extraordinario usted sabe que el aeropuerto de biarritz lleva cerrado va a estar cerrado un mes algo más de un mes por reparación en la pista

señora consejera es que estamos hablando de incompetencia flagrante a mí me encantaría como ciudadano venir aquí y decirle que bien va todo mire usted sabe cuánto cuesta un vuelo cuánto cuesta un billete de ida y vuelta a madrid por ejemplo de san sebastián usted ha sido diputada es verdad que los diputados nacionales

como es lógico no pagan el billete pero es que los pequeños empresarios los emprendedores los ciudadanos que quieren utilizar ese aeropuerto pagan un mínimo

yo entiendo que los diputados nacionales del partido nacionalista vasco y del partido socialista que viajan mucho a madrid los mismos que se oponen a ampliar la pista del aeropuerto

mire señora consejera yo creo que hay que apostar por las infraestructuras del país vasco

ahí están los diarios de sesiones y mi trayectoria en esta propia cámara he debatido

de verdad muchísimas veces y voy a seguir haciéndolo y voy a seguir reclamando que ustedes asuman sus responsabilidad que asuman

porque tienen y mucho por eso no se preocupe tanto de las competencias hagan y ejerzan las que ustedes tienen correctamente con determinación y dejen y permitan que otros no podamos llamarles incompetentes en la gestión

usted y yo y otros muchos pero usted y yo sabemos que si este aeropuerto si este aeropuerto

este aeropuerto sería viable y desde luego su actitud no sería la misma que la que está expresando aquí por estar en san sebastián esto lo sabemos eskerrik asko

el miércoles usted lanzó su campaña diciendo que quería

y no quería ser sucursal de madrid y su partido le dinamitó la campaña el mismo día

con la moción en el senado diciendo que no a esas transferencias que usted esa misma noche por cierto

pues hagan la transferencia porque me ponía el ejemplo de biarritz ya me gustaría ya me gustaría

gestión absolutamente descentralizada y en manos de las instituciones locales y usted lo sabe igual que yo está usted dispuesto a que su partido avale la transferencia de los aeropuertos de la gestión de los aeropuertos exactamente igual que biarritz esté en euskadi está usted dispuesto porque es un fleco es un fleco no es nada muy importante

lo gestionamos lo gestionamos de una forma diferente porque claro quien ejerce la competencia porque es de interés general solamente habla de ampliar la pista pero qué ha ocurrido

de excepcionalidad y se tuvo que declarar contra su opinión cuando estaban en madrid gobernando pero esa declaración de excepcionalidad ha decaído y se ha tenido que buscar otra alternativa quién la ha buscado ustedes cuando

sin ninguna capacidad según usted elaborar todos los informes llevarlos a madrid llevarlos a aena llevarlos a aesa para que se estableciera

y se consiguió por qué se desvían algunos vuelos porque no existe un sistema de guiado suficientemente adecuado

demostrar que es válido y que se ponga en funcionamiento un nuevo sistema para que esos aviones puedan aterrizar y puedan despegar en buenas condiciones por tanto señor sémper de verdad yo comprendo que es muy difícil para usted venir aquí con esta situación a defender un aeropuerto que es competencia suya pero no pero bueno competencia del estado durante muchísimo tiempo y usted habla

ha hecho mucho de lo que no le correspondía hacer y además con éxito permitan ustedes que ese fleco
venga a euskadi y podamos gestionarlo como el aeropuerto de biarritz y probablemente el resultado será absolutamente distinto eskerrik asko eskerrik asko tapia

eta egoera ikusi nahi den aldetik ikusita artolazabal sailburua ez da onargarria ayer mismo el diario vasco recogía la opinión de algunas

y comentaban que las residencias no tienen un personal suficiente que no es solamente un tema de la huelga que las personas que trabajan en esas residencias están asfixiadas decían tienen noventa y dos minutos

a una persona atendida en un centro en gipuzkoa noventa y dos minutos para levantar asear vestir ayudar a desayunar comer cenar cambiar pañales sacar a pasear

pero no es un problema de gipuzkoa este parlamento ha recibido también a la asociación de familiares

nos plantearon cuál era su vivencia en estos centros en agosto satse denunciaba la precariedad sanitaria en las residencias de bizkaia

por el aumento de las personas con altos niveles de dependencia y denunciaban que en algunas residencias no se ofrece atención permanente de enfermería las veinticuatro horas del día durante el año y pusieron el caso

en la que hay una única enfermera para atender a ciento cincuenta personas en el turno de noche eta

el decreto de servicios mínimos aprobado por el departamento de trabajo y justicia en relación a la huelga de gipuzkoa establece unos porcentajes que ponen esos ratios

del decreto actual y seguramente muy probablemente por encima de los que marca el nuevo decreto baina ez da hori bakarrik ez da dekretua ez dela eguneratzen

neutraltasun batean egon no se puede escurrir el bulto señora

los derechos al cuidado de las personas en situaciones de desprotección y cuando la igualdad no está garantizada esta es la cara b

así la ley sitúa a los servicios de atención primaria bajo la competencia de los ayuntamientos a excepción de la teleasistencia

el gobierno vasco por tanto asume las funciones de coordinar planificar y legislar así como la prestación de los servicios considerados dentro de su acción directa

personas trabajadoras es un tema delicado ya que una huelga protesta que altere la vida de los residentes afecta directamente a un colectivo muy vulnerable como es el de las personas mayores allí atendidas y a sus familias no solo los responsables institucionales sino toda la sociedad ha de preocuparse por la situación de esas personas allí atendidas y también de la condición laboral de quienes las atienden

lo hacen los responsables forales actuales y lo han hecho también hace años otras corporaciones el papel de la diputación en la negociación entre los sindicatos

por un convenio territorial es el de posibilitar ese diálogo para una solución y el de garantizar unos servicios que atiendan a esas personas mayores especialmente vulnerables

remitimos a esta cámara el borrador de decreto de centros residenciales para personas mayores

que deben reunir los centros residenciales para personas mayores en euskadi además de establecer las condiciones para su autorización de funcionamiento acreditación y homologación

el treinta de octubre del año dos mil quince entró en vigor el decreto de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales y en el anexo relativo a los centros residenciales para personas mayores se define el servicio y los objetivos así como las prestaciones

y la especificación de los restantes requisitos de acceso estableciendo qué está sujeto a copago dentro de este marco legal a través del proyecto de decreto se pretende regular los centros residenciales para personas mayores con la finalidad

unos servicios de atención residencial de calidad este proyecto de decreto se ha elaborado en estrecha colaboración con el personal técnico de las tres diputaciones forales con eudel

garantizar en primer lugar a las personas usuarias los cuidados y la asistencia personal para realizar las actividades de la vida diaria

en segundo lugar que las personas usuarias desarrollen con el apoyo necesario actividades orientadas a mantener sus relaciones con el entorno comunitario y a participar en el mismo en tercer lugar que las personas usuarias amplíen las relaciones con la familia y con otras personas residentes o ajenas al medio residencial y participen en la vida del centro y por último es el de favorecer su sentimiento de seguridad

son unos mínimos básicos fundamentales que deben guiar el desarrollo de la actividad y definición de cada servicio residencial

no solo se definen las cuestiones físicas o estructurales que debe tener un centro residencial para personas mayores también se establece un modelo de atención que se debe prestar en el mismo algo especialmente relevante así el modelo de atención aplicable en el centro tendrá los siguientes componentes básicos una atención integral y centrada en la persona el modelo de gestión evaluación y mejora continua de la calidad basada en la garantía de derechos

para el gobierno vasco constituye una prioridad que las personas disfruten del máximo bienestar los mayores en un envejecimiento activo y empoderado y toda la sociedad conciliando su vida personal familiar y laboral y siempre todo ello en igualdad

se desarrollaron muchas intensas jornadas de trabajo y tras un dilatado periodo de negociaciones

previamente trasladé a esta cámara su estructura y contenido básico en junio de dos mil diecisiete se inició el trámite de consulta pública previo a la elaboración del decreto

deriva del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas transcurrido el plazo fijado se recibieron veinte aportaciones y el proyecto fue aprobado con carácter previo por orden el veintiocho de julio de dos mil diecisiete

se modificó el proyecto de decreto para actualizar la normativa de referencia sobre protección de datos y en este momento el proyecto de decreto es estudiado por la comisión jurídica asesora de euskadi por la cojua que deberá emitir

en el plazo máximo de dos meses y este es el último plazo ya de su tramitación

las modificaciones que procedan a raíz del dictamen que emita la cojua será aprobado por el consejo de gobierno esperemos

en esta materia la fija la ley de los servicios sociales y es la de coordinar

si estamos cumpliendo con nuestra función de una manera permanente trabajando en la mejora permanente de los centros para nuestras personas mayores mediante la aprobación en breves meses de este decreto que de verdad se ha dilatado excesivamente en su tramitación dos años desde que yo

y que esperemos venga a mejorar y a consolidar un sistema que tenemos entre todos previsto eskerrik asko

ez dakit nola esan porque ya la he dicho que no se puede escurrir el bulto

aitortzea este gobierno tiene la posibilidad de empezar a afrontar los retos que tiene por delante como un gobierno y no como un consejo de administración guiado por criterios de mercado como un gobierno como un gobierno de un país decente que se guía por esa intención de cuidar y proteger a sus miembros guiado también por una justicia social de género de la que se pueden beneficiar todas las personas a usted señora artolazabal

sino poner a las personas en el centro a la vida en el centro ze artolazabal andrea erakundeak beste eragile ekonomiko bat bezala funtzionatzen hasten direnean

euskal herria bildu tiene clara su opción elevar a categoría política el cuidado de las personas y por elevación el cuidado de aquellas que las cuidan eta erakutsi dugu gainera

al señalar la necesidad de que esa mejora es precisa y en la que estamos volcados nosotros en el decreto que supera al anterior del año noventa y ocho hemos intentado

tanto en los ratios que se plantean como en el modelo de atención que es muy importante ese decreto estructura y ajusta de acuerdo con las exigencias reales del colectivo de personas mayores los mínimos materiales y funcionales que han de cumplir dichos servicios con el fin de garantizar el correcto ejercicio de los derechos de las personas usuarias

y nuestro objetivo es garantizar a las personas usuarias y a sus familias los cuidados y la asistencia personal para realizar las actividades de la vida diaria mantener su autonomía y fomentar el desarrollo personal mediante la adquisición de habilidades y evitar su deterioro en el proyecto de decreto de centros residenciales para personas mayores se define ese modelo de atención de los mismos donde se especifica que se hará de forma integral y centrada en las personas

de los gustos de las expectativas de futuro de cada una de las personas usuarias esta es la labor que nos toca como gobierno en el sistema vasco de servicios sociales planificar

esperamos que la definición y actualización del decreto de residencias sirva para mejorar la situación tanto a las personas que viven en las residencias como a las personas que trabajan en ellas nos consta que los responsables de la diputación se ocupan y preocupan de lo que suponen esas huelgas en los centros de atención a las personas mayores

la atención que las personas mayores y los profesionales que trabajan en ellas necesitan la mejora que hemos puesto en marcha con el decreto va a redundar en su bienestar en el bienestar de los mayores y en el de los profesionales que atienden y en general en toda la sociedad y sí que es verdad que en el ámbito de los cuidados tenemos un reto que abordar y ese reto lo vamos a abordar con la aprobación

en su elaboración esperemos que entre todos con los diferentes decretos con las actualizaciones seamos capaces de poder

una sociedad que ha evolucionado en la que las nuevas tecnologías las nuevas metodologías y la propia estructura social

debemos seguir dando pasos para promover la equidad y la cohesión social mejorar la calidad y la eficacia de nuestro sistema educativo para avanzar de este modo hacia la excelencia

no es la que usted dibuja usted habla de inclusión equidad igualdad de oportunidades euskaldunización autonomía condiciones laborales

eta berez ez gaitu kikiltzen nos enfrentamos a nuevos retos educativos

los pilares fundamentales que garanticen que nuestro sistema se adapte a los mismos con garantías de estabilidad es nuestro compromiso trabajar sobre un nuevo proyecto de ley vasco de educación sobre la base del acuerdo alcanzado que estructure y refuerce la estabilidad y la calidad de la educación vasca avanzando hacia la excelencia en las próximas décadas

a los retos de nuestro sistema educativo usted ha hecho referencia también a las condiciones laborales no me gustaría terminar mi primera intervención sin referirme al conflicto existente en los centros de iniciativa social de la educación concertada el gobierno este departamento

con las partes implicadas sindicatos patronal asociaciones de familias

compartimos la preocupación y desesperación de las familias me gustaría desde aquí instar de nuevo a las partes a que saquen el conflicto de las aulas es perfectamente compatible seguir negociando sin causar un mayor daño a los más de cien mil niños y niñas

ellos y ellas son los únicos perjudicados es necesario seguir trabajando para buscar una solución sin tener que perjudicar al alumnado

y todas para crear un clima de diálogo y acercamiento que posibilite la desconvocatoria de las nuevas jornadas de huelga planteadas

señora ubera se trata de trasladar una visión de cuanto peor mejor

como ya venimos diciendo de las últimas comparecencias y plenos aquí nada es casual y lo de hoy lo acredita también

eta indartzen duten alderdi guztien inguruan gogoeta bateratua egiteko dokumentua un documento fundamental y columna vertebral y básica para impulsar un nuevo proyecto de ley vasca de educación que sobre la base de dicho acuerdo estructure y refuerce la estabilidad y la calidad de la educación vasca avanzando hacia la excelencia en las próximas décadas

repito la mayoría representada en esta cámara aprobó ciento veintidós resoluciones tomando como base dicho documento ustedes decidieron no participar

no debatir ni votar ninguna de las resoluciones aprobadas ninguna ni a favor ni en contra ni abstención

dagoen gehiengoak más hechos señora ubera sin ir más lejos la semana pasada

y qué hicieron ustedes nada nada en ninguna de las tres propuestas de ley ni a favor ni en contra ni abstención directamente nada quién mira hacia otro lado cuando se trata de temas fundamentales de la financiación del sistema educativo recogidos en dicha ley podría continuar con más hechos sin ser reiterativa con respecto a por ejemplo las medidas complementarias de escolarización del alumnado inmigrante como son por ejemplo el nuevo decreto de admisión o los puntos de información en el proceso de matriculación en el marco del segundo plan de atención al alumnado inmigrante o las aulas de acogida de inmersión lingüística

o las medidas de estabilización de profesorado a través de las distintas convocatorias de empleo público además del cumplimiento de los acuerdos sindicales como puede ser la adjudicación de recursos

entre otras muchas acciones que se desarrollan desde el departamento todas ellas a favor de la mejora de la inclusión la convivencia la equidad del sistema y la mejora de las condiciones laborales

modu bat kultura eredu bat tienen que retirar esta medida inmediatamente porque se basa en una equivocada consideración de las artes

eventos de ocio y va en contra de una política cultural que debería favorecer un tejido social que forma parte del ser y de entender de nuestras vidas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades la cultura no son cruceros transatlánticos que atracan en el puerto de bilbao visitan el guggenheim y vuelven al camarote del barco ni tampoco lo son solamente los macroconciertos macroeventos y la gala de los mtv la cultura

hasta cuándo señor consejero van a seguir con políticas culturales que están llevando a nuestras ciudades y pueblos a no tener

describió el pueblo vasco como ese pueblo que canta y baila

y ustedes parece ser que quieren un futuro para nuestro país en el que se cante y baile poco

aburrido y es que usted están haciendo bueno aquello que cantaba eskorbuto de mucha policía normativas decretazos prohibiciones sanciones y poca diversión se quiere imponer un decretazo el año que vuelve la polla

que exclamaba el otro día que dónde mierda va a empezar un grupo si no es en un bar eta la polla dator eta berri txarrak badoa baionan

eskerrik asko mahaiburu andrea señor arzuaga este un falso debate al que usted me quiere llevar

usted que no puedo entrar quiere usted que yo como consejera de seguridad compare hechos delictivos que son

diferentes resoluciones absolutamente dispares hechos delictivos que ni en su origen ni en su motivación ni en su resolución

seguramente a usted le hubiera gustado que se compararan entre sí

puede ser así pero esa no es tarea ni suya ni mía no nos compete a ninguno de los dos

falso debate de terrorismo sí terrorismo no cuando sí cuando no porque sí porque no

juega usted con ventaja porque puede desequilibrar la balanza en un sentido o en otra

o hacia otra en función de lo que más le convenga y seguramente su gente se lo aplaudirá seguramente puede usted equiparar

que son similares generar duda respecto a si son equiparables o no sin necesidad de más exigencia que su propia apreciación pero los procedimientos de investigación policial y también los procesos penales

porque han evaluado porque han interpretado hechos porque es exactamente lo que aparece en el atestado del servicio de investigación criminal territorial de álava es decir

pone en la audiencia nacional concretamente en el caso de los dos jóvenes y vamos a dar la literatura de este atestado porque hablan de violencia callejera hablan del zulo de durana hablan de elementos para la de artefactos explosivos y armas típicas

artefactos explosivos y armas típicas de la kale borroka

yo estoy próximo al cuánto qué proximidad tienen ellos habla

a una organización que ya no existe atención método de conservación de materiales bidón de plástico hermético que ha sido históricamente usado por los comandos de eta es decir utilizar un bidón de plástico hermético es vincularse a comandos de eta

esto es un despropósito señora beltrán de heredia principio de realidad

o próximas al terrorismo etarra han continuado con el hostigamiento y acoso hacia ciertos sectores de la sociedad

atestado hasta cuándo han continuado con este hostigamiento

este documento y sigue como hechos más graves se podrían enumerar principalmente el acaecido en la localidad navarra de altsasua donde el clima hostil hacia los agentes de la guardia civil es papable clima que más adelante en este informe de ertzaintza se atribuye usted sabe qué hace siete días se ha tomado una decisión en este parlamento

altsasua mostrando de solidaridad con estos jóvenes y denunciando esta interpretación de terrorismo que se estaba haciendo porque usted ampara ahora estos términos

caza de brujas esto es persecución en estado puro no son antecedentes delictivos es persecución ideológica lo hechos que hipotéticamente se les están atribuyendo usted mismo los calificó en el dos mil catorce de procesos internos que tenían vinculación con procesos internos de kutxabank y en cambio lo comparamos sí lo comparamos con un tiroteo

su bala pasó a sesenta centímetros del dueño de esa casa y porque aquí se está aplicando

la ertzaintza como policía integral es la responsable de nuestra seguridad de la de todos y la de todas

a garantizar la seguridad ciudadana y a velar por la convivencia pacífica y a proteger a las personas y a los bienes y cuando investiga un presunto

evidencias que puedan incriminar si en función de esas evidencias se deriva

de lo que encuentra y derivado de ello el código penal establece alguna catalogación de esas es decir que pueden darse circunstancias o actuaciones relacionadas con algún tipo calificado como de terrorista así se lo hace saber al juzgado y también a la fiscalía la decisión judicial no siempre coincide con la primera atribución o clasificación que hace la ertzaintza pero precisamente en estos casos en ambos dos casos

esta confirmación tanto por parte del juzgado natural como por

han corroborado esa calificación inicial puede que a usted no le guste puede que sí puede que no veo que no pero este es el hecho y este es el hecho

en álava existen ya más de veintisiete salones de juego abiertos ante la inminente apertura en el barrio de zabalgana muy cerca del instituto a trescientos metros de un nuevo local de apuestas señora beltrán de heredia qué medidas se van a tomar

para limitar la apertura de estos salones de juego y casas de apuestas cerca de centros escolares

compartimos la preocupación por las consecuencias del juego descontrolado e irresponsable como lo hemos manifestado en varias ocasiones y desde la administración y en concreto desde el departamento de seguridad

la constitución del observatorio del juego precisamente la semana pasada hemos abogado por regular por controlar por prevenir y por alertar sobre los peligros del juego irresponsable y de las ludopatías somos conscientes también de las necesidades de seguir controlando los indicadores de una actividad tan sensible también dinámica y tan cambiante con relación a los salones de juego

un tope de licencia para todo euskadi doscientos diez licencias con una distancia entre los salones de juego de quinientos metros

todas las licencias posibles incluidas la del salón al que usted hace referencia y por qué porque su

pero también tengo que insistir en que contamos con normativas explícitas que prohíben la entrada de menores a los salones de juego

el propio reglamento de juego y la ley de espectáculos y

hay que regular sí hay que ser exigentes en el control del cumplimiento de esa normativa sí es necesario estar atentos a los riesgos para adoptar las medidas de prevención

pero no es bueno generar alarmas cuando tenemos mecanismos de control que pueden garantizar y pueden evitar esos riesgos eskerrik asko

la estructura de los barrios en nuestra comunidad ha ido mutando con el paso del tiempo y por completo con la proliferación

la consecuencia ha sido la desaparición de los comercios tradicionales sobre todo en los barrios más pobres donde existe mucho desempleo y problemática social

no existen fíjese quién se beneficia con el juego media docena de empresas que ni crean empleo ni sus beneficios revierten en nuestra sociedad con el obvio engaño de ganar dinero rápido

y que poco después perderán de una forma u otra de eso se trata de ganar al principio para perder casi siempre el juego se ideo precisamente así

a costa de los más desgraciados y no podemos señalar

de la oferta de juego y apuestas que ha llegado también a las calles de nuestros municipios en euskadi

y centros escolares con la consiguiente exposición de los alumnos y las alumnas y la normalización de una actividad que puede desembocar en problemas de adicción

que están ahora mismo abiertos dónde se concentran nos parece además

convocando y llevando a cabo protestas en los barrios tanto las asociaciones de vecinos como asociaciones de jóvenes

colectivos y ahora en vez de limitar la apertura de estos espacios cerca de centros escolares se va a producir la inauguración de un nuevo salón de juego

a trescientos metros de un instituto público porque ustedes que sí tienen competencia y que sí tienen capacidad han decidido no limitarlo y regularlo

señora bertrán de heredia no es suficiente con la realización de un diagnóstico no es suficiente

hay que ir más allá hoy en día el fenómeno del juego es una lacra el panorama es desolador en gasteiz el veinte por ciento de la gente que acude a asociaciones

son menores de veinticinco años un porcentaje que ha crecido a la vez

y se ponían de moda las apuestas deportivas y hay que añadir que el dos por ciento de las personas que buscan ayuda son menores de edad encima no permitamos que cerca de sus centros

del juego en plataformas digitales medios de comunicación y cartelería incluso en estadios municipales donde entrenan

están sometidos a un bombardeo constante no solo eso también en marquesinas de autobuses y nos parece increíble que esto

porque se copan espacios publicitarios con las caras más populares del momento

en personas cada vez más jóvenes la posibilidad de probar suerte

tomar medidas y abordar desde las instituciones planes campañas y medidas concretas que palien el impacto negativo del juego es sencillo defendamos los derechos de los colectivos más vulnerables como los jóvenes y no los intereses económicos

regular controlar seguir midiendo para poder planificar mejor investigar analizar hacer un diagnóstico del impacto del juego ese es precisamente objetivo del observatorio del juego así lo exigió el propio parlamento

no de ley que aprobaron el pasado jueves por tanto dejemos que el observatorio haga su trabajo

de los salones de juego a los centros escolares es cierto pero tampoco respecto a otros centros centros cívicos residenciales deportivos religiosos sanitarios parques de esparcimiento en cambio sí tenemos establecidas las distancias mínimas entre los locales de juego y sobre todo tenemos unas prohibiciones clarísimas

evidentemente para su observancia actúa la unidad de juego y espectáculos y el personal

también las policías locales a las que se ha formado en este ámbito academia de arkaute realizan esta actividad con todas las dificultades que pueda plantear esta regulación sin embargo es una regulación fácil sencilla

y probablemente no tanto por lo que afecta a menores que también por eso regular y penalizar sí nos compete hacerlo y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo pero también hay que implementar otras líneas de trabajo otros aspectos como es el de la responsabilidad familiar la educación

y vamos a trabajar e implementar también esas líneas de trabajo entre otras cosas con campañas por el juego responsable

y en todo caso como decía dejemos trabajar al observatorio que haga un diagnóstico exacto del problema de la situación

no medidas a botepronto sino con una visión general

señora san josé cuál es el grado de avance en la elaboración así como implementación del acuerdo alcanzado por el parlamento vasco a partir de la moción denominada administración de justicia violencias machistas

eskerrik asko presidente anderea eta eguerdi on guztioi señora arana en el departamento de trabajo y justicia tomamos

aprobaron el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete le aseguro que con total convicción estamos trabajando como lo hacíamos antes de ser aprobada esa moción en todos y cada uno de los puntos de la misma

en cuanto a la implementación hemos intensificado las líneas de trabajo y mejorado los servicios estamos implementando medidas en diferentes líneas

nuestras actuaciones van dirigidas en tres direcciones proveer de medios a la administración de justicia dotar

facilitar a las víctimas condiciones que permitan evitar la revictimización respecto al apoyo de la administración de justicia estamos ofreciendo a todos los miembros de la judicatura formación sobre violencia de género y se están cubriendo inmediatamente las bajas de personal y se conceden los refuerzos necesarios en los juzgados de violencia sobre la mujer

recibiendo formación específica en relación con las víctimas se están reforzando los servicios de colaboración con la justicia a través del servicio de atención a la víctima con la creación del servicio de acompañamiento integral que permite una dedicación individualizada para cada caso

integral que junto con el equipo psicosocial judicial son los que emiten los informes periciales

en el reciente decreto de asistencia jurídica gratuita hemos incorporado medidas que vienen a fortalecer la atención a las víctimas como la exigencia de que sea un letrado o letrada el que se haga cargo del caso en todo el proceso judicial

al del resto conscientes de la importancia que tiene la atención a niños niñas y adolescentes en lo que llevamos de legislatura hemos inaugurado un nuevo punto de encuentro familiar en bilbao y creado otros tres

a usuarios menores y familiares también estamos trabajando para adecuar en los edificios judiciales espacios destinados a las víctimas de violencia de género condiciones en las que se evite revictimización una de las claves fundamentales para que la justicia sea más eficaz es dotarle de los medios necesarios a la judicatura por ello hemos solicitado la creación
de un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en bilbao que espero que sea autorizado por el ministerio de justicia eskerrik asko eskerrik asko

ese día en su intervención expuso que en el caso

constató que había realizado una visita y que había vivido o había dado constancia de que las malas condiciones generaba situaciones tensas e incomprensibles tanto en los juzgados especializados como los mixtos o en el juzgado penal de bilbao y que había valorado caso y que estaban adoptando medidas

aprobada por mayoría y que entre las medidas se pedía elaborar un plan de implementación de las recomendaciones derivadas

que se identifican como necesarios para asegurar el acceso a la justicia de mujeres niñas y niños adolescentes víctimas de violencias machistas

y bien han pasado cuatrocientos ochenta y tres días de esa moción y no tenemos ningún plan no hemos tenido constancia alguna de su existencia no está publicado en ningún sitio

durante ese tiempo siguen aumentando el número de denuncias señora san josé denuncias por violencia de género ejercida por pareja expareja y también por desconocidos

también para concienciar y dar la respuesta adecuada y permítame señora san josé que le recuerde que a día de hoy seguimos sin dar una respuesta adecuada seguimos los deberes es una irresponsabilidad sensibilizar y generar mecanismos para la denuncia para que luego no estén los medios suficientes para no revictimizar o lo que es lo mismo no ejercer violencia institucional debemos de responder y atender bien tener los medios suficientes asegurar la no repetición y por supuesto reparar la situación de la administración de justicia debe preocuparnos y ocuparnos

se lo dije hace dos años y se lo digo hoy primero están sobrecargados y la sobrecarga genera dinámicas de trabajo que tienen como principal consecuencia que las situaciones no puedan

no son las adecuadas lo que conlleva situaciones como por ejemplo

y el agresor se puedan incluso ver

además en los numerosos casos en los que la mujer tiene que acudir acompañada por niños y niñas los espacios terminan siendo totalmente inadecuados se lo dijo

emakunde la situación señora san josé de la administración de justicia es un claro ejemplo

pero los hechos no dedicar los recursos necesarios para que sea real y efectiva la situación de los juzgados es lamentable y además le están venga a decir que tiene que hacer una formación integral a todo el personal

las mujeres denuncian y luego se encuentran con una justicia ciega y que no les da una respuesta nosotros vamos a continuar trabajando en el impulso de medidas concretas para que este panorama desolador que vulnera el derecho de acceso de justicia a las mujeres mejore

señora arana en mi primera intervención con los límites de tiempo que tenemos

desde luego como socialista tengo convicciones claras sobre la lacra que supone la violencia y las medidas que hay que tomar para

y tengo la seguridad que con el consenso y el acuerdo sobre todo entre las fuerzas progresistas es que son imprescindibles estos acuerdos para avanzar en la protección de las víctimas les propusimos un proyecto de presupuestos que incrementaba sustancialmente las partidas destinadas a mejorar la atención de las víctimas de violencia contra la mujer

comprobar la partida destinada al convenio para aumentar los letrados y letradas que

a la violencia contra la mujer el servicio de atención a la víctima este servicio de acompañamiento integral a las víctimas en los juzgados qué solucionaría no solamente el problema

nosotros mostramos nuestras prioridades ustedes

pero a pesar de esa actitud negativa vamos a trabajar para sacar adelante nuestras propuestas me alegro que desde luego

contemos con su consenso y con su acuerdo para llevarlas adelante eskerrik asko eskerrik asko